recordando que los socialistas vascos siempre hemos defendido que la mejor política antiterrorista la mejor política para defender las libertades la democracia el estado de derecho y la convivencia era la política que surgía del máximo consenso el máximo consenso posible

éticos y democráticos básicos sobre principios firmes y políticas eficaces en la última legislatura aparcando intereses partidarios aparcando protagonismos

asentar acuerdos en esta línea y ahora seguimos pensando exactamente lo mismo seguimos pensando que la mejor política

para conseguir cerrar definitivamente el ciclo terrorista y asentar

es aquella que se hace desde el máximo consenso desde el máximo consenso desde la firmeza democrática

y la defensa de principios éticos y democráticos compartidos es la que se hace desde una verdadera política de memoria verdad y justicia para que nunca se olvide el daño el sufrimiento

seguimos defendiendo que la mejor política para las víctimas

y la escucha de las víctimas del terrorismo desde los poderes públicos y también desde los responsables políticos los socialistas pensamos que es precisamente la defensa y el impulso de valores de tolerancia de pluralidad de respeto al diferente el rechazo de actitudes totalitarias y violentas

que le dieron cobertura al terrorismo es el mejor instrumento

el mejor camino para evitar que se vuelvan a repetir actitudes totalitarias es

el mejor camino para construir una sociedad decente lehendakari cuando usted y su gobierno tomaron posesión le ofrecimos diálogo y negociación

en la política que había que hacer para conseguir cerrar el ciclo terrorista y asentar la convivencia queríamos y queremos que usted y su gobierno acertaran

que los consensos que tejimos con muchas dificultades y con mucho esfuerzo en la legislatura pasada se han roto que hoy tenemos menos consensos que ayer y esto lehendakari a nosotros nos preocupa y a usted también debería preocuparle y debería reconocer que algo se está haciendo mal desde el gobierno cuando esto pasa

hay menos consensos que ayer hoy tenemos menos consensos que ayer porque es evidente que muchas de las propuestas que el gobierno reflejó y concretó en el plan de convivencia

se podría decir que solo las comparte el partido nacionalista vasco y es verdad que se me puede decir que

y que se recogieron sugerencias pero siendo leales y serios

esas sugerencias no fueron tomadas en cuenta y no se tuvieron en cuenta porque el plan tenía un objetivo fundamental que era conseguir lo que se llamaba desde el mismo los micro acuerdos a cuatro

dulcificaba la realidad tenía un lenguaje que desde luego no era claro y contundente y eso era un problema de inicio muy difícil de superar y nosotros compartimos que siempre es bueno ampliar consensos

pero lo que en ningún caso vamos a hacer es confundir que el objetivo son los consensos sacrificando principios básicos para nosotros lo importante son los principios no los consensos hoy señor lehendakari muchas víctimas así lo han dicho

que lo estaban en el pasado las discrepancias surgidas en el seno de la secretaria de paz y convivencia que han culminado con la destitución del señor urkijo

por ellos mismos como la discrepancia sobre la política que había que hacer y creo que debería reflexionar sobre algo que es importante

de conseguir consensos entre cuatro o cinco personas que formas parte del equipo de la secretaria de paz y convivencia tendrá probablemente más dificultad para asentar consensos

llevar a usted a reflexionar y yo le pido que no traslade a la oposición como han hecho algunos miembros de su gobierno

no señor lehendakari ha sido usted el responsable de diseñar la estructura de la secretaria de paz y convivencia de designar a sus responsables

el responsable del cese del señor urkijo pero a nosotros nos preocupa el contenido el contenido de las políticas que hace el gobierno por eso

a recomponer los consensos a liderar la recomposición de los consensos que tanto nos costó tejer en el pasado

de conseguirlos fue pieza fundamental para conseguirlos le emplazamos

esos consensos se hagan desde la firmeza democrática se hagan desde el cumplimiento estricto de lo que hemos acordado

ético y democrático básico que todos menos algunos hemos compartido y aprobado en este parlamento le emplazamos a hacer

que todavía hoy existen y dan justificación y amparo al terrorismo le emplazamos a buscar caminos para que entre todos podamos recomponer esos consensos a liderar una verdadera política eficaz no de intenciones que permita cerrar lo antes posible el ciclo terrorista y asentar la convivencia

sobre valores éticos y democráticos básicos no para construir una sociedad de olvido para construir una sociedad ética y democráticamente sana hacer una política sí

a las víctimas una política de entendimiento que refuerce los consensos

sobre estas cuestiones nunca vamos a hacer bandera política cuando sea necesario como hoy diremos con claridad lo que pensamos pero sabe que puede contar con nosotros

imprescindibles y necesarios para acertar sí acertar en la política que hay que hacer y lamento tener que decirle que la orientación

en este tiempo no es la adecuada y lo que es peor los resultados

por lo tanto la responsabilidad de lo que hay que hacer lehendakari es especialmente suya y sabe que si

biktimarekiko gertutasuna atentzioa eta gainontzekoak ahaztu egin dituela hau da eskatzen da hacer una política de cercanía atención y escucha en contraposición se supone a lo que está sucediendo de lejanía y desatención que no se dice en qué solamente se alude al genérico

y cuando se dice retomar parece que ha habido una situación de abandono o desvío desde nuestro punto de vista esto además de ser

es injusto porque no se corresponde con la realidad ni de los hechos ni de la gestión del lehendakari en primera persona o de la secretaría de paz y convivencia y las víctimas también certifican y verifican esto que estoy diciendo

pues tengo que decir que parece que upyd no está tan solo como algunos pretendían señalar desde el comienzo de la legislatura yo he estado muy atento a los discursos de los diferentes grupos especialmente y en esto

a los grupos del partido popular y del partido socialista nosotros criticamos en su momento la elección del señor jonan fernández

el plan de paz y convivencia denunciamos la falta de cercanía a las víctimas del terrorismo por parte del actual gobierno vasco no reclamábamos gestos sino políticas denunciamos la falta de un lenguaje claro por parte del lehendakari por parte del señor jonan fernández y por parte del gobierno vasco en relación a esta cuestión

denunciamos también la falta de un discurso que pudiera deslegitimar

todo esto lo llevamos diciendo desde el comienzo prácticamente de la legislatura se nos acusó de quedarnos prácticamente solos también en aquel momento

bueno ahora algunas de estas cosas las hemos escuchado no solamente al señor barrio

señor ares la elección de jonan fernández el plan de paz y convivencia la falta de cercanía a las víctimas la falta de un lenguaje claro o la falta de un discurso que deslegitime el proyecto político de eta y efectivamente

y llevamos pidiéndolo prácticamente en solitario desde hace año y medio desde el comienzo de la legislatura cuando observamos que los primeros pasos eran claramente

creo que el gobierno vasco debe tener presente y no lo tiene el significado político de las víctimas del terrorismo y esto es presente

político de eta que algunos siguen defendiendo y esto es presente

tiene que defender evidentemente la derrota definitiva de eta esto es presente en lugar de pedir

o acercarse permanentemente a las reclamaciones y las exigencias de la izquierda abertzale deberían ustedes marcar una frontera

entre los que somos demócratas y quienes no lo son y ustedes esto no lo han hecho y esto yo no sé si es política antiterrorista pero esto es política en defensa y en defensa de la democracia y esto le falta evidentemente al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco

pero esto ha sido así históricamente en el caso del partido nacionalista vasco y en el caso de este gobierno desde el principio esto no es nuevo desde la destitución del señor urkijo como alguno pretende plantear esto lleva así

de la legislatura el partido nacionalista y el gobierno vasco pretenden blanquear diluir la existencia de eta tenemos a un gobierno que vive de espaldas a las víctimas del terrorismo que no las atiende como merecen

a los presos de eta o a las reivindicaciones de la izquierda

en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo no son gestos lo que exigen y lo que exigimos nosotros es un cambio de rumbo una cercanía del gobierno

no lo ha habido no es que lo diga upyd es que lo han dicho ellas especialmente en los últimos tiempos por lo tanto el gobierno vasco también tendrá que escuchar lo que diga

lo que le ha dicho el señor maneiro tendrá que atender ha hablado de consensos el señor ares

el consenso entiendo yo con los partidos políticos democráticos tienen que elegir o la izquierda o buscar ese consenso imprescindible con los partidos políticos democráticos de esto en definitiva se trata por lo tanto se trata de cambiar

elegir un nuevo equipo para que todo esto sea posible esto es lo que pedimos en la transaccional hau da gure mozioak eskatu nahi duena

lo que debe hacerse si no se hace todo esto no habrá

de esa convivencia que necesita la sociedad vasca gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta mire señor arzuaga a mí no me interesa lo que usted diga

sino porque no me interesa esencialmente usted tiene una gran asignatura pendiente y en ese sentido descalifica desde mi punto de vista

a usted le ha parecido bien que existan víctimas de eta y eso no lo ha rectificado porque le ha gustado y le gusta que haya existido eta

con lo que estábamos hablando pero a mí sí me interesa y mucho lo que diga y lo que piense el gobierno y lo que piense el lehendakari y el partido nacionalista vasco y por eso esta iniciativa que traemos

de acuerdo la convivencia exige esfuerzos y responsabilidad ética

y algunos y quizá la secretaría de paz y convivencia están rebajando las exigencias a quienes aún no han dado esos pasos previos y eso lo hemos detectado señor egibar no sé qué

pero yo le ruego que responda a la autenticidad y al compromiso ético y no a que ustedes sigan apuntalando

orientada a ese mundo orientada a bildu permanentemente señor egibar estábamos hablando del presente no del pasado

que el papel de la secretaria de paz y convivencia no ha sido coherente con su título

había dicho que ha faltado sensibilidad con muchas aportaciones recibidas muchas al documento inicial del plan y que se recordaban muchos olvidos en esas aportaciones

utilización de encuestas para criticar al gobierno de españa en una actitud que no creo que era la de la secretaría de paz y convivencia precisamente haciendo honor a su nombre ha habido apoyo a planteamientos y actuaciones de extraños intermediadores y verificadores que han tenido patéticas actuaciones recientemente en este país y que todos hemos sido testigos

y eso es presente una deficientegestión con problemas añadidos a asociaciones en relación con subvenciones con aportaciones económicas a quienes trabajan por los derechos humanos

subvenciones y no respuesta a esas necesidades ha habido y vuelvo a decir actuaciones

y colaboraciones y aportaciones económicas a asociaciones que no se la merecen como etxerat señor

yo no voy a decir que ha habido una organización de un club de fans de otegi pero ha habido una defensa de alguien que la justicia ha condenado

y ahora le recordaba finalmente la falta de gestos de alguien denunciados por alguien que ha estado trabajando en la secretaría

general o en la secretaría de paz y convivencia esas son las cuestiones ese es el presente señor

y ustedes son los que tienen que reaccionar ante esa insatisfacción porque ustedes están en el gobierno señor urkullu

las riendas yo creo que usted ha minusvalorado el papel que esa secretaría debiera tener en unir a los que rechazan la violencia

o a los que la tratan de ocultar el papel de la secretaría debiera ser

y de la disolución de eta y eso no se ha planteado como objetivo estratégico señor lehendakari ustedes tan amigo de planes estratégicos no han hecho uno de verdad en relación con el final

han perdido una oportunidad en el plan aprobado que ha sido un plan insuficiente un plan equidistante y vuelvo a decir no sé qué propondrá el señor

en su segundo turno en relación con estas cuestiones a las que se ha referido y hay cuestiones a las que ustedes

que desde el instituto universitario de historia social valentín de foronda se hicieron al plan

de la universidad del país vasco redactaron una serie de aportaciones

en el plan se declara en varias ocasiones la intención de no equiparar violencia sufrimientos de víctimas

son un conjunto de elementos situados en un mismo plano sin gradaciones donde las responsabilidades parecen equipararse a pesar de lo apuntado

y por lo tanto no parece importar el contexto ni los hechos políticos ni en definitiva la historia que tanto nos ayudará a comprender lo sucedido yo creo que ha habido grandes olvidos señor lehendakari

tendrá tiempo desde luego habrá que trabajar por el consenso o por el acuerdo pero hay algunas cuestiones previas que ustedes tienen que resolver en relación con algunas exigencias

me dice que no le interesa lo que yo diga señor barrio no me interesa lo que usted diga pero me preocupa mucho lo que usted y su partido hace porque todavía

políticas violentas porque no tienen un planteamiento no nos traen un programa que coadyuve a la convivencia a la justicia o a la verdad en este país y

precisamente hemos conocido cómo desde el gobierno que usted representa aquí se mantiene la denegación o se adentra por esa senda de negación de reconocimiento de las víctimas del terrorismo de estado algo que sí me preocupa y de lo cual vamos a tener que hablar

adoptar decisiones en esta cámara el señor ares apelaba a máximos consensos sin embargo se iba a la legislatura anterior se remite a aquella legislatura que está pasada y

llegar a esos máximos consensos pero para eso es necesario la voluntad de la otra contraparte para

constatamos ustedes no la tienen habla de inmensa mayoría del parlamento le decía

en su enmienda menciona también la inmensa mayoría del parlamento en criterios principios

no lo sé si podríamos estar de acuerdo con ustedes porque evitan el simple ejercicio de hablar y tal vez llegar a una nueva síntesis que precisamente entendía yo que era la lógica y la dinámica que se pretendía poner en marcha dentro de la comisión

puede haber nuevas mayorías señor ares y si usted además decide quedar fuera de ellas pueden llegarse a nuevas mayorías que decidan avanzar

para buscar consensos porque no queremos permanecer maniatados esperando a quien no quiere conseguirlos egibar jaunari bai

entre ustedes y el partido nacionalista vasco que es lo que han buscado siempre poder

ya lo sabemos y además sabemos sobre qué postulados sobre qué principios sobre qué bases quieren construir ustedes ese futuro lo hemos discutido muchas veces aquí y ese es el principal problema sobre el que

ese es el principal problema que nosotros estamos dispuestos a ampliar consensos también a que se incorpore en grupo de eh bildu pero siempre

ética y democrática y la defensa firme y contundente de los principios éticos y democráticos básicos que acordamos con mucho esfuerzo toda la legislatura pasada sin rebajarlos

desde nuestro punto de vista y en todo caso acépteme algo escúcheme objetivamente señor egibar señor lehendakari hoy hay menos consensos

a los socialistas eso nos preocupa y a ustedes debería preocuparles hoy este debate y la votación que tengamos

será la confirmación lehendakari de lo que estoy diciendo de que hay menos consensos

y a nosotros nos preocupa y a usted debería preocuparle

a eso le emplazamos porque es muy importante porque si no se escucha no se atiende es difícil resolver los problemas y hoy si se escucha no digo que tengamos que hacer o que el gobierno tenga que hacer la política que siempre proponen las víctimas del terrorismo pero hoy

descontentas desconcertadas con el gobierno vasco que lo había hace unos años y esa es una realidad y es una responsabilidad que le corresponde al gobierno para recomponer esa situación si no se atiende a la realidad

y ya sé se lo he dicho antes que el objetivo fundamental del gobierno vasco son los micro acuerdos si lo dijo el secretario de paz y convivencia con claridad y contundencia

es que para nosotros los micro acuerdos que nos proponen solo serían posibles conseguirlos rebajando los principios éticos y democráticos que hemos

nosotros nunca vamos a anteponer consensos sacrificando acuerdos sacrificando valores nunca lo vamos a hacer

porque será más fácil que podamos entendernos y mire señor arzuaga nosotros queremos mirar al futuro

la convivencia con todos pero queremos hacerlo sobre valores éticos y democráticos básicos que todos deberíamos compartir y me reconocerá que se haría mucho más fácil poder construir el futuro juntos

lo que usted también ha llamado terribles años de plomo que eran asesinatos un día sí y otro también por parte de la banda terrorista eta

y en los medios de comunicación que el terrorismo nunca tiene justificación y mucho menos en democracia

nosotros todos los de eta los del gal

ustedes especialmente los de sortu reconocen que su apoyo

ha sido una terrible equivocación que contribuyó a un daño

será más fácil que juntos construyamos el futuro será más fácil que podamos mirar al futuro sin olvidar pero para construir el futuro juntos mientras no lo hagan comprenderá

en el pasado señor ares yo he dicho antes en euskera que

convivir es algo más que coexistir no es que existamos al mismo tiempo somos parte de una sociedad tenemos que resolver un problema de convivencia el propio plan aunque referido

socioeducativo habla también de un compromiso para prevenir precisamente de lo que puede ser el dogmatismo el fatalismo el maniqueísmo y hasta el sectarismo

eso te previene del dogmatismo no somos poseedores de la verdad absoluta

convivir es aprender a promover las oportunidades entre las dificultades hombre previene del fatalismo también convivir es asumir

previene también del maniqueísmo y finalmente dice que convivir es comprender el valor superior del respeto a la dignidad humana pues previene

nos hemos referido a los principios que deben alimentar y permitir la construcción

relato del pasado que va a conllevar necesariamente la asunción de responsabilidades teníamos tres principios planteados que se proponen en ese microacuerdo

de ese microacuerdo que nos pueden servir perfectamente para una valoración compartida del pasado cada cual desde su propia e intransferible

diferente la responsabilidad de unos y otros a la hora de analizar el pasado y se propone una propuesta de compromiso político para un marco de confianza en el presente pues bien para que el conjunto de la cámara lo sepa y por extensión también la ciudadanía desde aiartza

los parlamentarios del pnv pasando por la presidencia de la cámara el propio lehendakari

a que el fin de la violencia de eta no suponga pasar página sin clarificación reconocimiento ni crítica explícita sobre lo sucedido

a que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegadas por una mirada al futuro que se olvida del pasado nos comprometemos a no rescribir una historia justificadora de la violencia o las vulneraciones de derechos humanos

y a rechazar su uso nos comprometemos a que sin equiparaciones todas las víctimas

reciban el reconocimiento y la reparación que merecen nos comprometemos a que el fin de la violencia no se transforme

y vertebración social de la convivencia nos comprometemos a que dentro del marco de posibilidades legales la normalización social aborde la cuestión de los presos y la política penitenciaria de un modo acorde a la nueva realidad social y finalmente nos comprometemos a que el fin de la violencia suponga

y haga posible un proyecto un proceso y un programa de encuentro social principios y compromisos al menos del grupo nacionalistas vascos para construir la paz y la convivencia el

quiere compartir ese camino las bases están expuestas eskerrik asko egibar jauna

sí gracias presidenta este es quizás un asunto poco mediático

relevancia por lo tanto yo les pido que vuelvan a sus escaños porque estamos hablando vamos a hablar

vamos a hablar de posibles corruptelas vamos a hablar de posibles pactos políticos para colocar a determinados amigos de algunos y vamos a hablar de opacidad o sobre todo de falta de transparencia y les hablo

que es una empresa participada por el gobierno de españa en un cincuenta por ciento por el gobierno vasco en un veintidós coma cinco por ciento

en un cinco por ciento queremos saber qué es lo que ha ocurrido en esa empresa

en los últimos años y no vamos a parar hasta poder saber qué es exactamente lo que ha ocurrido ahí es decir independientemente del resultado de esta moción no vamos a parar para poder saber qué es lo que ha ocurrido en esta empresa lo cierto es que hace

control realizamos una interpelación al gobierno que respondió el señor erkoreka en relación a los trabajos realizados por esta empresa desde su

relación a la situación de sus trabajadores y en relación especialmente a los dos adjuntos a la gerencia que durante este tiempo ha tenido esta empresa

el gobierno vasco en aquella interpelación y ustedes lo recordarán

y la escucharon no respondió absolutamente a nada no aclaró absolutamente nada y obviamente de ahí esta moción que hemos el gobierno podría haber aportado algún tipo de dato podía haber dicho que lo que había aparecido en algún medio de comunicación era falso podía haber aclarado alguna cuestión podía haber dado su versión lo cierto es que no aclaró prácticamente nada y por lo tanto estamos obligados a presentar y a defender esta moción qué es lo que yo le dije

qué es lo que habíamos leído en algún medio de comunicación en relación a esta cuestión el veintidós de enero de dos mil catorce se decía que

sin ir a su puesto de trabajo la inspección de trabajo dependiente del gobierno central investiga desde noviembre al ex alto cargo del partido nacionalista vasco

sin ir a trabajar un inspector ha realizado ya diversas actuaciones sobre la actividad laboral de juan cruz nieves quien fue diputado foral vizcaíno de urbanismo y director gerente del consorcio de transportes

el día treinta de enero de dos mil catorce también leímos que fue despedido

sin trabajar el ex alto cargo del partido nacionalista vasco que ha cobrado de una empresa pública cerca de doscientos diez mil euros sin ir a trabajar

este jueves en concreto tres días después de que registráramos nosotros una interpelación sobre la cuestión al día siguiente vimos publicado

limitado de momento de este asunto los grandes medios no se han hecho eco leíamos que el ex alto cargo del partido nacionalista vasco que cobró doscientos diez mil no devuelve el dinero

no le van a exigir el dinero al menos de momento la empresa pública va a esperar al informe de la inspección de trabajo que investiga el caso desde noviembre para ver qué hace el uno de abril de dos mil catorce leemos que trabajo sanciona al ex alto cargo que cobró doscientos diez mil euros sin ir a trabajar

ha confirmado las irregularidades el acto de inspección ha sancionado tanto a juan cruz nieves

a nieves le obliga a devolver las cotizaciones a la seguridad social de esos tres años y a la empresa

por lo que considera una infracción muy grave al día siguiente leemos que el gobierno deberá aclarar el caso

presentamos la interpelación la segunda interpelación que presentábamos son informaciones gravísimas crean alarma social y por lo tanto nosotros quisimos preguntar al gobierno qué era lo que pasaba ahí si esto que habíamos leído era cierto si estos datos son reales

que contara su versión nada hizo sobre la cuestión también leímos que el informe constata que el alto cargo ha percibido desde febrero de dos mil once

euros brutos anuales esto en relación

leemos que el informe de la inspección también confirma las irregularidades del predecesor de nieves

pero no hay ninguna actuación porque al haber transcurrido más de cuatro años queda prescrito se trata de otro destacado miembro del partido nacionalista vasco el ex director de radio euskadi y del diario

durante la etapa en que estuvo en el puesto entre abril de dos mil ocho a septiembre de dos mil nueve

la entrada de nieves en la sociedad se produjo como fruto de un pacto político en dos mil once entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi para buscar una salida al ex alto cargo ante lo que iba a ser su inminente

y alguna información sobre la cuestión hemos recibido al parecer habría habido un pacto político entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista

ni el gobierno de españa ni el gobierno vasco ni la diputación ni el ayuntamiento de sestao se hayan

a nosotros no sé a ustedes nos parece ciertamente sorprendente inexplicable o quizás explicable pero en términos que algún o algunos partidos políticos puedan o no quieran aceptar en todo caso ahí está la moción qué es lo que plantea la moción instar al gobierno de españa al gobierno vasco a la diputación

a aclarar aquí en el parlamento vasco la situación laboral en la que se ha encontrado la plantilla de ibarzaharra desde su creación hasta el momento presente

sus sueldos y la labor que desempeñaron durante el tiempo en que ejercieron sus cargos así como los trabajos desarrollados por dicha sociedad que vengan aquí

es lo que pensamos y también proponemos instar al gobierno vasco a publicar en un apartado destacado de su web institucional de modo permanente y actualizados periódicamente y en aras a conseguir la máxima transparencia y el acceso sin trabas

una serie de datos relativos a cada una de las entidades que forman parte del sector público de euskadi y a cada una de las entidades participadas por el propio gobierno vasco para saber qué es lo que se ha hecho qué se hace qué contrataciones hay qué sueldos hay en cada una de las empresas públicas que existen en euskadi

de que las empresas públicas muchas de las empresas públicas existentes bastantes empresas públicas de las existentes se utilizan son utilizadas

para colocar a lo que podríamos denominar sus excedentes políticos en un momento determinado en fin creo que la iniciativa

se debería haber sido votar a favor de esta moción no entiendo que alguien pueda oponerse a lo que aquí se plantea y por lo tanto es lo que pedimos

saber la verdad de los hechos ocurridos puesto que todos ustedes quieren y están a favor

por unanimidad como decía al principio no vamos a parar hasta saber qué es lo que ha ocurrido está pendiente la comparecencia de la propia consejera en este parlamento que creo que se ha pospuesto no sé si en más de una ocasión incluso nosotros hemos registrado ya varias solicitudes

hemos pedido la comparecencia de los adjuntos a la gerencia de ibarzaharra hemos pedido la comparencia del actual presidente de la empresa

ustedes los conocen mejor que yo hemos pedido también la comparecencia del inspector de trabajo autor de la inspección en esta empresa hemos pedido

y pediremos tantas comparencias como sean necesarias para como ayer en una carta anónima se nos pedía no
de insistir en esta cuestión porque aquí hay mucho de lo que hablar y mucho que descubrir gracias eskerrik asko maneiro jauna

aurreratu nahi dugu aldeko botoa emango diogula gaur talde mistoak ekarri duen mozioari se nos presentan en dicha moción dos puntos que nos parecen correctos

en la empresa ibarzaharra y que tras esa inspección imaginamos se proceda en caso de que así se vean necesario a la petición de devolución de ese dinero cobrado de manera fraudulenta

a través de este punto tampoco y por adelantarle la información que usted demanda en este punto ya ha sido solicitado por euskal herria bildu tanto

como en el ayuntamiento de sestao información que todavía no se nos ha remitido aun teniendo en cuenta que hace tiempo que ya que esa solicitud se realizó

transado previamente y que hoy se nos vuelve a se nos devuelve el punto tal como se presentó en la iniciativa y no cuál fue el resultado de dicha transacción

lo que ha acontecido en dicha empresa ya ha sido relatado y ya es de sobra conocido por todos y todas las que estamos aquí por lo que no

el fragante uso abusivo y fraudulento del dinero público ningún grupo pudiese

y restitución del dinero que ha sido mal utilizado en este caso se utilizó para pagar un sueldo a una persona que en ningún momento desempeño por lo que parece

esta persona realizó fraude y como tal debe tratarse este tema por lo que como mínimo las instituciones públicas implicadas deberían reclamar la devolución integra de ese dinero

que habrían sido estafadas por el señor nieves ya que de lo que hablamos es de un fraude que ha sido pagado con dinero público y así entendemos que debe hacerlo por iniciativa propia el gobierno vasco actuando de iniciativa propia y demandando al señor nieves la devolución de ese dinero

pactos políticos para recolocar a personas que abandonan la actividad política pública

de empresas participadas e incluso de empresas privadas en los cargos directivos los ejemplos nos sobran estos últimos meses las noticias al respecto han sido continuas tres ejemplos voy a dar el caso de miguel como primer caso

que hoy estamos tratando aquí ya que a día de hoy solo sabemos que ocupa un puesto en una empresa pública tampoco sabemos

las funciones por las cuales se dice que ha sido contratado o ha sido readmitido dentro de su puesto de trabajo por otro lado estaría el caso que hoy nos ocupa y que posiblemente

con el que se justificará toda la inactividad que se ha sufrido hasta ahora

sino quizás deberíamos preguntarnos también la razón por la que otras dos personas cobraban un salario que no venía justificado por actividad laboral alguna

ya que directamente dejó de ir a su puesto de trabajo y para finalizar

del ebb como consejero delegado de repsol de las consecuencias de dicha designación nos iremos dando cuenta en el futuro no me cabe ninguna duda

que nos genera es para los intereses y en base a los intereses de quién trabaja esta es la política de las puertas giratorias que venimos denunciando constantemente

es la política de los intercambios de cromos del oscurantismo y de los posteriores casos de corrupción a nadie se le escapa que existe un clamor ciudadano

y por ello debemos realizar un análisis exhaustivo de la realidad de todas las entidades que conforman el sector público vasco y de todas aquellas empresas participadas por el sector público en las que por lo menos se puedan realizar la consignación de consejeros

la credibilidad ante la ciudadanía en la labor que realizan las empresas públicas ya que da la impresión de que son instrumento de colocación más que una herramienta

acerca de la necesidad de tener un sector público fuerte y sobre el que no recaiga ningún tipo de duda por ello creemos necesario el control y fiscalización constante de todo lo que conforma el sector público horregatik aurkeztu dugu

honako hau dio zuzenketa horrek el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que realice conjuntamente con las inspecciones de trabajo de los tres territorios históricos

que forman parte del sector público de la comunidad autónoma del país vasco y de cada una de las entidades participadas por el gobierno vasco a fin de conocer y descartar

y presente dicho informe en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta moción a consecuencia de interpelación nahiko nuke zuzenketa hori ondo azaltzea eta ondo

gardentasun alorrean oinarria en ningún momento pretendemos poner en duda

más bien todo lo contrario pretendemos que todas aquellas personas que ocupan puestos dentro de las empresas públicas sin realizar trabajo alguno porque es evidente que existen sean

de que ese dinero sea restituido a las arcas públicas y se saque de los bolsillos de aquellos que reciben con dichos trabajos el pago atrasado

quien puede abordar hoy por hoy dicha fiscalización de trabajo son los organismos correspondientes tanto del estado como aquí en euskal herria por ello solicitamos que lo hagan conjuntamente

existen y la tardanza de los entes públicos en denunciar o solucionar estos sucesos podría hacernos pensar y así sucede que no existe voluntad para desvelar estos contratos fraudulentos o estas colocaciones fraudulentas

pedimos la inspección completa desde la inspección de trabajo y desde el gobierno vasco a través de sus competencias inspecciones y fiscalizaciones de todas las personas que ocupan puestos en dichas empresas y las que han sido designadas a través de los órganos públicos todos los grupos deberíamos aceptar que sería

y las empresas en las que se participa con ello seríamos conscientes incluso de si dichas empresas públicas o participadas están sobredimensionadas por culpa de personas

políticos para no realizar acción ninguna ni labor ninguna en dichas empresas públicas quizá la cuestión del tiempo que pedimos sea una cuestión que pueda ser difícil de cumplir estamos hablando de que solicitábamos

ese sería el menor de los problemas no pondríamos pega alguna a que en vez de seis fuesen doce o quince meses el problema lo situamos en la actitud pasiva que hoy se asume no podemos esperar a que sean los medios de comunicación quienes destapen estos hechos

quien realice esa denuncia y solucione el problema ibarzaharraren kasua icebergaren punta izan daiteke ala ez

otro lado no fiscalizar y no tomar medidas fiscalizar

existe ahora mismo por ello pedimos que tomen en consideración la enmienda que les hemos presentado por ello les pedimos que voten a favor de nuestra enmienda de adición

para empezar recordar algo que es importante cuando se plantean estos temas y es que

hace mucho tiempo hemos presentado varias iniciativas

muy deprimida y reclamamos hoy aquí que esos trabajos se aceleren en consonancia

a iniciativa nuestra porque es ahora mismo lo que más importa

que presenta upyd plantea que se aclaren distintas como hemos visto distintas

adjuntos hay en medio un acta de la inspección que concluye

de asuntos que son inasumibles son inaceptables y si es que eso es así solo falta para tener la opinión definitiva que la autoridad laboral

cuáles han sido los hechos y cuáles son las sanciones

una opinión ya ajustada por ahora el asunto está

nos parece la propuesta de upyd adecuada porque la ocupación del parlamento una de las ocupaciones principales debe ser

por el buen uso del dinero público controlar el uso del dinero público y eso es algo que cuando se presenta

y buscando aclararlo ciertamente esto planteado así no deja ya mucho campo a la discusión puesto que se inicia

en la cámara sobre estas circunstancias sobre todo como digo a partir de que tengamos una resolución

pero dada la gravedad del asunto tengo que aclarar algo que nos afecta a los socialistas de lo que dijo el portavoz del gobierno en el último pleno de control

porque se acaba de repetir muchas veces que ambas personas

y juan cruz nieves son militantes destacados del partido nacionalista vasco

pero el señor erkoreka argumentó que esa contratación la de estas dos personas

a esa militancia a que hubieran ocupado importantes cargos públicos en representación de ese partido sino que la contratación de iñigo camino como adjunto a la gerencia la hizo un consejo de administración de ibarzaharra estoy citando al portavoz del gobierno enel que seis de los diez miembros

dirigidas por el partido socialista en este caso

en dos mil ocho los máximos responsables de las cuatro administraciones propietarias

firmaron un acuerdo marco previo a la constitución de la sociedad en él se estipulaba y sigue en vigor

hoy sepides propone al gerente para su contratación y sprilur es decir el gobierno vasco propone al adjunto a la gerencia

y se sigue haciendo en cumplimiento de un acuerdo en vigor absolutamente legal en dos mil ocho como le correspondía el gobierno vasco dirigido entonces por el pnv propuso a iñigo camino adjunto a la gerencia no fue

erkoreka se ha confundido en el segundo caso en el de juan cruz nieves en dos mil once dirige el gobierno vasco el partido socialista pero al poder proponer también el gerente por dirigir también

la elección del adjunto a la gerencia para que no determine los dos cargos operativos el mismo partido y la diputación propone al gobierno vasco

en febrero del dos mil once y eso es algo normal

que hacen los organismos públicos las administraciones y a mí no me parece en estos términos que sea ni extraño ni perjudicial el que distintas administraciones empleen razonablemente sus capacidades para tener todos una representación que haga que fue el objeto cuando se constituyó

al que me refería que haga que haya una representación de todas las instituciones en la ejecución de los acuerdos en el gobierno de la empresa aquí

pero el problema es que parece ser que esas dos personas no fueron a trabajar y esto sí que no se puede aceptar si es que es así no fueron a trabajar

el veintinueve de julio de dos mil once solo unos cinco meses después de la contratación de juan cruz nieves el gobierno vasco envió una carta al consejo de administración pidiendo explicaciones sobre el cumplimiento laboral de esa persona habían pasado muy pocos meses los consejos de administración en fin no se hacen todos los meses

inmediatamente se envió una carta pidiendo esas explicaciones y en respuesta a esa solicitud en la siguiente reunión del consejo el letrado asesor de ese consejo

con todos los gerentes que sigue con todas las administraciones trabajando en todos los periodos informó de que el adjunto a la gerencia cumplía con sus obligaciones pero que

que sus funciones no requerían presencia física en las oficinas por el momento con lo que el gobierno aquí tiene la opinión de la empresa

otra fórmula o no tiene por qué desconfiar de eso ahora resulta en este momento que la inspección de trabajo investiga y levanta

pues bueno cuando veamos como decía la resolución definitiva podremos ver los términos justos de este asunto que en cualquier caso de la manera que está desarrollando es muy grave y por eso debe aclararse

en agosto del año pasado solo decir que josé luis marcos merino al que se citó en ese pleno de control envió una carta advirtiéndolo en enero de dos mil trece

al menos por la comunicación de marcos merino siguió trabajando y hasta

ya saben ustedes por terminar de aclarar que desde enero de ese año del dos mil trece ya no hubo representantes de ninguna administración gobernada por representantes del partido socialista por eso vamos a apoyar la iniciativa que presenta upyd porque persigue aclarar esta

que pretende instar a la empresa a que cumpla las resoluciones firmes

pero queremos enfatizar que tenemos que atenernos a las investigaciones oficiales y a las sanciones si las hubiera o no de esas investigaciones en cuanto a la primera parte de la enmienda del partido nacionalista vasco entendemos que se queda corta porque compartimos que tenga esa intención de aclarar pero se refiere únicamente a una de las instituciones

por lo tanto hay muchas formas de informar y nosotros mantenemos la del proponente que nos parece suficientemente amplia y con respecto a la enmienda de eh bildu

hace un planteamiento que entendemos inabordable en su extensión ineficaz además digo que es inabordable razonablemente

todas las entidades participadas por las administraciones públicas en euskadi y hay que tener en cuenta que entre sociedades entes fundaciones organismos autónomos públicos o participados hay unas cuatrocientos cincuenta y dan empleo

personas aproximadamente sin embargo solo hay unos sesenta inspectores que se encargan del resto de las empresas de la comunidad de la prevención de riesgos de

que esto se haga en seis meses de una forma absolutamente indiscriminada entendemos que no hay

que soporte una investigación indiscriminada sobre un sector amplio y que además no debe abandonar el trabajo por supuesto

más que razonable porque en fin si me permite la expresión matar hormigas a cañonazos las cosas se investigan concretamente y hasta el fondo pero

con carácter público participado o no de la comunidad es un empeño

yo llego allí y les pregunto están todos no están puedo mirar y si uno no está me pueden decir oiga es que

fiscalizan documentos concretos es muy difícil dedicar ese esfuerzo de esta forma

y por eso no podemos apoyarla no discutimos la intención pero yo creo que

en el sistema y para la segunda parte de la moción que es muy importante también que es la de la transparencia tendré que reservarme para el segundo turno pero tengo que decir algo la transparencia

queremos ejercerla hoy aquí una vez más los socialistas apoyando la moción que se presenta sino que es algo que ha dado un salto cualitativo importantísimo en euskadi en la pasada legislatura en la legislatura socialista porque nos encontramos con que era la penúltima

en el régimen de transparencia y cuando acabó recibió un premio de criterio internacional por haber pasado a ser la segunda del estado
reyes jauna amaitzen joan mesedez sí presidenta ahora mismo

enorme dado gracias a actuaciones iniciativas pioneras en euskadi como irekia open data o el portal de transparencia incorporado a la página

tranpa politikoa esto es tramposo desleialtasun politikoa

yo no voy a entrar a describir ni a relatar cuál fue el origen de ibarzaharra ni tampoco su trayectoria

y los distintos logros que se han producido hasta el momento porque entre otras cosas eso ya fue objeto de discusión como decía ahora mismo

que fue aprobado por unanimidad y que precisamente insisto

en nuestra enmienda lo que sí quiero decir es que el único pacto que existe es un pacto institucional como ha relatado el señor reyes por el cual el gobierno del estado en la sociedad ibarzaharra propone el nombramiento la persona para ser nombrada gerente de la sociedad

la propuesta del nombramiento del adjunto al gerente desde ese punto de vista es lo que ha ocurrido comoocurre en otros muchos ámbitos sin ningún tipo

segundas o terceras lecturas el señor nieves y todo esto me vale también para el señor camino fue contratado en febrero del año dos mil once fue contratado porque tenía

que eran absolutamente necesarios para el momento en el que fue contratado

las diferentes tramitaciones sufrieron sus retrasos su trabajo consistía en apoyar al gerente en estos temas así como la de

si me apuran el señor nieves es natural de trápaga por lo tanto

conocía perfectamente en situ cuál era la situación de

futuro parque empresarial la decisión fue unánime y no se confunda señor reyes de la misma manera que usted dice la verdad el señor erkoreka también dijo la verdad porque aportó un dato por tanto verdad por verdad efectivamente al adjunto gerente lo propone sprilur y también el dato que aportó el señor erkoreka cierto y la aprobación de los nombramientos se realizó por unanimidad el señor nieves participa asesora gestiona hace un seguimiento de las actividades de la empresa

en las que expone y propone ideas y soluciones estudia y analiza la documentación soporte de los proyectos a desarrollar busca alternativas etcétera participó

y contribuyó al desarrollo y evolución del proyecto prueba de todo ello son las actas del consejo ya se ha nombrado aquí alguna en mayo del dos mil once

el gerente el consejo de administración toma razón de que el adjunto a gerente de la compañía sigue desempeñando las funciones encomendadas de gestión y representación el veinte de octubre lo ha leído el señor reyes se dice a través del letrado

el adjunto a gerente continúa desarrollando las funciones que recoge su relación laboral con la compañía no requiriendo las mismas tareas presencia en las oficinas por el momento al constituir dichas funciones cometidos de gestión y representación y proyección exterior pero es que el diecinueve de diciembre

el gerente de la sociedad expone al consejo que el adjunto al gerente reporta a la sociedad con una periodicidad semanal

activamente en el funcionamiento de la sociedad por lo tanto participa asesora gestiona de una manera activa y hace un seguimiento de las actividades de la empresa y no hay ningún misterio más aquí señorías uno y otro

fueron contratadas conforme a los procedimientos establecidos en

legalidad desarrollaron su trabajo y ejercieron su responsabilidad conforme a las directrices del consejo de administración

de acuerdo a las condiciones que se les establecieron tanto en el contrato

insisto consejo de administración y gerencia porque trabajar y no nos confundamos trabajaron fue un trabajo real y no

para terminar desde luego nosotros como grupo parlamentario también hablando

y del propio partido nacionalista vasco mantenemos nuestro compromiso claro y firme con sestao

adecuado al desarrollo económico y a la creación de empleo en un municipio como el de sestao
que ha sido tan duramente y que están siendo tan duramente castigado por el paro amaitzen joan berehala

para la instalación de nuevos proyectos salir de la crisis supone y exige el compromiso de todos y generar proyectos sólidos de futuro los objetivos de ibarzaharra siguen siendo válidos y pedimos a todos

gracias presidenta buenos días señorías consejero

la sociedad ibarzaharra se crea en dos mil siete con el objetivo de activar estimular

y muy particularmente en los municipios de sestao y del valle de trápaga trapagaran

favorecer e impulsar el desarrollo económico de ambos municipios proporcionando las condiciones que permitan contar con una oferta de suelo urbanizado

y con la construcción de edificaciones destinadas a actividades empresariales

y la promoción de nuevas empresas en el ámbito indicado y con ello recuperar

del sestao y del valle de trápaga trapagaran municipios como ya se ha dicho especialmente castigados

del veintiséis por ciento la tasa más alta de euskadi este proyecto tenía que a ver estado acabado en el dos mil once

de la totalidad de las actuaciones no será superior al año dos mil once así consta

pero no se acabo en ese fecha como tampoco estaba finalizado en marzo del dos mil doce

se produce un cambio de consejeros y entran representantes de este partido por la parte participada

en ella se pide que las situaciones laborales de la plantilla de ibarzaharra y muy especialmente la de sus dos exgerentes adjuntos contratados en el año dos mil ocho y en el dos mil once se aclara en el parlamento

y la presencia física porque también se está aquí hablando de presencia física que no siempre es

tengo que comentarlo y todos señorías tenemos informaciones que nos llevan a pensar que dos de las contrataciones en esta sociedad

anteriormente están digamos entre comillas bajo sospecha pero compartiendo que lo oscuro hay que aclarar

máxime en cuestiones tan sensibles como estas en las que se han podido producir conductas inadecuadas es más que deseable es más que deseable

para aclarar esta cuestión y se depuren las responsabilidades si las hubiere si como supongo ese es el objetivo de la iniciativa

de varios miembros del pnv los dos cuestionados y también está pendiente la comparecencia de un miembro del partido socialista de euskadi personas todas ellas que han ocupado puestos en la sociedad

para que den las informaciones que ellos dispongan sobre la situación laboral de los dos exadjuntos a la gerencia que son los dos contratos digamos

así mismo también está pendiente según anunció el señor erkoreka cuando fue interpelado la comparecencia en comisión de la consejera señora tapia para informar de forma monográfica

de prudencia y de responsabilidad que tendremos que tener en cuenta en nuestras manifestaciones y en nuestros pronunciamientos cuestión ha sido no solo objeto de la inspección de trabajo

traslado de la misma a la fiscalía por si los hechos pudieran ser constitutivos los

pudieran ser constitutivos de delito pero señorías todavía no hay nada firme y señor maneiro que pinta mal

pues sí que tampoco parece ético pues también ahora bien con las cautelas que tenemos que tener en una cuestión todavía no aclarada

no firme y que en tanto no se resuelva definitivamente

y respeto a las actuaciones de la fiscalía desde nuestro grupo creemos necesario que se aclare qué es lo que ha pasado

y por tanto creemos también necesario que se sustancien las comparecencias que están pendientes para que podamos tener una mayor información con las explicaciones de los comparecientes por cierto señor lópez de munain usted también lo decía porque usted

pero luego de repente ha dicho por lo que parece hoy me ha dejado un poco más tranquila

y luego ha dicho por lo que parece hablaba de fraude por lo que parece y también lo decía el señor reyes el asunto está en trámite

no hay resolución todavía todos estamos de acuerdo en que hay que aclarar esta situación y que hay que aclarar el uso del dinero público

parece lo suficientemente serio para así requerirlo como también para plantearse como ya lo estamos haciendo y esta mañana se ha dado un avance en esta cuestión

el que este tipo de empresas tienen que tener mayores controles por lo que se hace necesario establecer regulaciones que las dote de una mayor transparencia en información pública

tenemos una ley de transparencia aprobada e impulsada por el gobierno del partido popular aquí estamos a la espera de que esto se ponga

contaba con su voto y con el voto favorable de todo el grupo popular no sé si finalmente no va a ser así

votada de manera favorable al menos por el grupo popular y resulta que finalmente no va a ser así y no me explico por qué no van a votar a favor de esta moción

más información y que están pendientes determinadas comparecencias que tienen que producirse en las próximas semanas pero es que esta proposición no de ley lo que pretende es que haya más comparecencias para que haya más transparencia

no sentenciamos nada lo que hacemos es pedir la comparecencia de determinadas personas de determinados gobiernos para que nos aclaren qué es lo que ha ocurrido de hecho alguna solicitud de comparecencia la registramos el mismo día que esta proposición no de ley

solicitud de comparecencia registrada no votan a favor de esta moción me decepciona profundamente pero ustedes verán en todo caso

de pedir las comparecencias y de hacerlo a través de una moción el objetivo era digamos

el parlamento una mayoría del parlamento y no sea solamente un grupo quien pida la comparecencia de determinados gobiernos o determinadas personas digamos tengan menos fuerza en el caso de que pretendan no comparecer ese es el objetivo de que hayamos incluido aquí estas solicitudes de comparecencia yo por lo demás quiero agradecer

a favor de esta iniciativa claro el partido nacionalista vasco habla de deslealtad habla de trampa política cuando lo que proponemos es una iniciativa concreta para que haya mayor transparencia en el sector público societario pero qué problema hay aunque hayamos debatido esta cuestión hace un año

alcancemos esa mayor transparencia más teniendo en cuenta que esta ley de administración pública vasca que el gobierno plantea presentar no va a incluir a todas las empresas participadas por parte del gobierno y nosotros pensamos que sí que debería incluirse a todas pero qué problema hay en que se pueda colgar en la web

a todas estas empresas públicas creo que la sociedad lo exige yo sí hablo de fraude yo sí hablo de corrupción

yo sí hablo de malversación de fondos públicos y yo sí digo que existen empresas públicas que se han convertido y han ejercido en los últimos tiempos como agencias de colocación yo sí hablo de esto y lo digo ya que alguno pretende

hablamos de fraude corrupción amiguismo malversación de fondos públicos presuntamente claro por supuesto que sí pero ya está la inspección de trabajo ahí diciendo que ha habido irregularidades

en todo caso que los señores camino y nieves vengan y lo expliquen vendrán o no vendrán esa es la cuestión y la duda

y nos lo expliquen y que vengan los gobiernos y nos los expliquen y que vengan

que nos lo expliquen cómo es que nadie se dio cuenta en aquel lugar de que había personas con un sueldo altísimo que no iban físicamente al trabajo

nos lo aclaren nosotros hemos presentado aparte de esta moción ya digo

a este parlamento cuanto antes por lo demás agradecer a los grupos me ha parecido interesante

debutó él también lo recordará mejor que yo en esta cámara

en contra de una iniciativa creo que fue nuestra para redimensionar el sector público societario y en aquel debut que usted tuvo y que recordará perfectamente

incendiario acusando prácticamente al resto de grupos de acabar o de pretender acabar con todo lo público en euskadi ahora es curioso pero usted lo que plantea es que existan inspecciones y fiscalizaciones para la totalidad de las empresas públicas existentes me parece un buen paso pasar de

el mantenimiento opaco de multitud de empresas públicas que no ha servido más que para colocar a los amigos de algunos a pues dos años después

llevar a cabo una inspección y una fiscalización de todo ese sector público societario en fin esperemos que la aprobación de esta moción sirva para aclarar las cosas que es lo que upyd busca gracias

señor maneiro cuando usted habla de la defensa que mantuve en aquel pleno sobre el sector público la vuelvo a realizar

en contra de las privatizaciones de la defensa del empleo público y también

todas aquellas contrataciones que se habían hecho a dedo de personas que pasan del ámbito de la representación política pública al ámbito de las empresas

o sobre lo que también criticamos y hablamos en aquel pleno

hoy en día porque no se trata de cuestionar el sector público sino lo que se trata en definitiva es de cómo se realizan dichas contrataciones o dichas

contrataciones a dedo por parte de determinados partidos políticos no tenía intención de bajar pero ha sido una de las palabras que ha dicho

se nos exige al resto de los grupos responsabilidad con este caso

no sé cómo decirlo pero lo que habría que tener

sino aquellos que sabiendo que se estaba haciendo mal no han hecho absolutamente nada durante años porque quienes han avocado a que esa situación o que esa empresa esté en las condiciones que está y que no se haya sustanciado

en dicha empresa no ha sido culpa de las personas que hoy estamos reclamando más información para nada la responsabilidad en todo caso recaerá sobre el consejo

o de dirección estaban representadas una serie de entes públicos algunos de ellos controlados por ustedes que

esa misma responsabilidad es decir lo que nosotros y nosotras no somos culpables ninguno de los grupos aquí es de la situación económica de la zona y lo que no se puede achacar y encima uniendo lo mismo es

que bastante hay con lo que hay igual la pregunta es al revés es decir no hayan ustedes pagado doscientos diez mil euros a una personas por no ir a trabajar

es haber hecho un trabajo serio esa es la diferencia luego en relación a la enmienda que hemos presentado desde eh bildu

pero lo que es evidente es que podremos afinar en la segunda porque si se trata simplemente de definir si los entes participados son solo o pueden serlo en aquellos en los que ponga

en el consejo de dirección simplificaríamos bastante más y lo reduciríamos mucho el concepto que se supone que es problema por el que ustedes

al igual que me imagino que si los órganos públicos tomasen una actitud no pasiva de control sobre la situación laboral de estas personas

como se ha visto vienen de unos pactos políticos entre dos grupos políticos que ni uno ni otro quieren acabar con dicha situación lo que yo no entiendo es como ustedes no hicieron un relato previo es decir antes de que les pillen por lo menos sepan qué van a decir para que no se echen la culpa unos a otros de haber quién está teniendo la verdad sobre el tema al final la verdad es de ambos y el problema es que ambos hicieron un pacto político que al final

es a hablar de si al señor nieves le ponen una estatua de piedra o de bronce en la plaza de su pueblo eskerrik asko

estoy de acuerdo en que el impulso tiene que ser urgente

pero ahora nosotros no estamos en el consejo de administración

que aprueben cuanto antes no el proyecto de urbanización

porque sino eso se va a alargar y aparte que se

eso no va a acabar de arrancar nunca luego aplíquense ustedes el partido popular en poner en marcha algo

señor maneiro efectivamente nosotros vamos a votar a favor porque se trata de esclarecer lo que pasa que

usted que suele medir incluso las provocaciones me ha parecido un poco antisistema porque ha compartido la necesidad de analizar de forma indiscriminada con carácter general ha achacado

en fin un mal funcionamiento o unos malos modos en cuanto a las contrataciones a mí eso

me parece injusto no es cierto y no favorece ni a la política ni a la cosa pública en cuanto

no es cuestión de verdad o de mentira lo importante no son

sino el sentido que se les da al articular el discurso

el señor erkoreka cuando dice que la mayoría eran responsables del partido socialista está induciendo si se lee toda la intervención

y en cualquier caso la verdad en el sentido de verdad de comprensión de un hecho que para eso estamos aquí es que el acuerdo marco establece quién

claramente con lo cual ha sido

del pnv el nombramiento de iñigo camino claramente y el otro también señor

de munain yo no puedo con usted de verdad me irrita muchísimo

en mi caso o dice unas cosas que son absolutamente indecentes

que hay un pacto político pero un pacto político no institucional sino un pacto político vergonzoso que puede llevar a perjuicios no ha podido en esta tribuna decir

para hacer no sé qué estrategia y como no puede dice parece mentira que ustedes no se hayan puesto de acuerdo oiga usted es y no lo voy a decir pero es que

pero es que utiliza la maledicencia la falta de rigor el exceso solo para buscar fines políticos

juegan con las palabras para justificar lo injustificable o sea que déjese de historias y baje de una puñetera vez

a hacer política decente es decir a reclamar lo que quiera pero con argumentos sólidos dentro de medidas razonables para poder aplicar

atacando a los demás o personalmente o colectivamente cuando no tiene ni argumentos ni razones ni pruebas para hacer lo que hace pida las aclaraciones que quiera pero deje de insultar señor maneiro en ese sentido

y efectivamente compartimos lo que hay

en su moción

para sugerir al gobierno que el anteproyecto va a venir pero

en transparencia que gran parte del contenido de su propuesta está ahí pero no nos hemos molestado ni en enmendarlo porque bueno pues cúmplase cúmplase y hasta

para anticipar medidas voluntariamente la administración y avanzar en la transparencia desde hoy mismo y por supuesto le pido al gobierno que se aplique no en traer proyecto de ley a esta cámara

lo que dice la ley básica en transparencia se cumpla antes de diciembre o en diciembre que es el plazo es que no vemos mucha marcha en las páginas web del departamento en ese sentido

algunas cuestiones que apunta en su moción el señor maneiro respecto a la transparencia

en la ley básica no están pero eso no es óbice en este tipo de normas para que

se aplicaran y se adelantaran luego por lo tanto por lo que nos interesa a todos esperan los ciudadanos y nosotros hemos demostrado que queremos aplíquese en la transparencia de manera urgente intensa y eso sí se lo pido formalmente

ratifico en calificar su actitud de tramposa en relación al segundo punto de la moción es una actitud

política evidentemente la gestión de ibarzaharra no corresponde y en ese sentido tiene toda la razón a eh bildu ha correspondido al partido socialista y al partido nacionalista vasco y en estos momentos al partido nacionalista vasco

no hacemos dejación de ningún tipo de responsabilidad ni tratamos de endosar la responsabilidad a otros yo simplemente hacía ese llamamiento

repetirlo creo que es necesario lanzar ese mensaje en la línea del texto que aprobamos el pasado trece de noviembre por unanimidad pero sin tratar de

en este caso la denuncia existió es decir que inspección de trabajo del gobierno vasco actúa bajo denuncias y usted dice que no existen bueno en este caso existió yo le pediría al señor reyes que no se obsesione tanto con el señor erkoreka que me parece que

porque efectivamente hubo un pacto institucional y no tiene nada de malo que haya un pacto institucional pero mediante ese pacto institucional señor reyes no se me enfade

el gobierno del estado propone

propone a la junta a gerente y decide el consejo de administración

bien por supuesto en el espíritu de la proposición no de ley adoptada el pasado trece de noviembre absolutamente de acuerdo con que tenemos que impulsar ibarzaharra etcétera pero ustedes también tuvieron responsabilidad es decir no quiero entrar en ello y eso lo he soslayado

aludiendo a esa transaccional pero usted sabe que el proyecto urbanístico tenía que estar terminado para el dos mil once y se terminó en el dos mil trece

el acta de inspección ha sido recurrida por tanto no es que no sea firme es que no es absoluto firme un acta de inspección un tanto rara pero bueno

qué es lo que da de sí lo que sí me quiero referir es

usted profusamente señor maneiro despliega en esta cámara algo de eso ha tenido el señor lópez de munain se lo digo con todo cariño que luego ha echado el freno pero

es muy malediciente su técnica es la de aproximarse al tema

evidentemente las que no le interesan para su interés particular

a continuación hace preguntas lanza preguntas interrogantes y sin esperar a ningún tipo de respuesta lo que hace es

el pnv no se lo va a admitir y no se lo va a admitir porque en política como en la vida no todo vale y no es permitible calumniar

mediante una interpretación torticera de lo que pasa una interpretación maliciosa atentando así al honor y a la dignidad de las personas

y la política de la sospecha y la maledicencia puede esconder informaciones falsas hechos semiciertos bromas burlas propaganda pero tiene como gran desventaja que los aludidos no se pueden defender ahora

y sus efectos tienen si cabe mayor impacto el ingenuo rumor de antaño es ahora una herramienta política

los valores de la honestidad la sana competencia y el verdadero debate político con parámetros de decencia actuar de esta manera
señor maneiro es ir contra cualquier principio ético gracias eskerrik asko

gracias presidenta señor maneiro no nos dé lecciones no nos dé lecciones por favor

le pido coherencia seriedad y responsabilidad y abandone esa actitud que yo llamaría maniquea porque en este momento no vamos a apoyar su moción

no somos malos ni somos corruptos ni no queremos esclarecer la verdad no está en posición de la verdad iba a decir de casi nada como ninguno estamos pero en este caso usted es de una beligerancia

un exceso y no voy a hacer mención a determinadas cosas que ya se han hecho menciones pero sí voy a decir

del partido popular en el cincuenta por ciento que le corresponde como sociedad participada por el gobierno de españa que es

porque nos ha tocado arreglar todo lo que no funcionaba que era mucho y poner orden hico falta señorías que entrasen los representantes del partido popular en la sociedad ibarzaharra para

que ustedes estén informados de esto empezando por cerrar una oficina en la gran vía de bilbao

hizo falta que entrasen para proponer para denunciar que no era necesario mantener el puesto de adjunto a gerente esto es

porque además había que llevar a cabo una revisión de los recursos humanos de la sociedad y también se puso de relieve por parte de estos representantes

de un letrado que hasta entonces prestaba sus servicios que no era apropiado tampoco la aportación anual a una sociedad deportiva que se hacía que tampoco era apropiado realizar pagos en publicidad no solo por el precio

sino que es que además esta opción estaba fuera de la estrategia comercial de la sociedad y todas estas cuestiones señorías se pusieron en evidencia y encima de la mesa ya en el consejo de administración de junio del dos mil doce

gobierno de españa indicar la extrema necesidad la urgencia que había de proceder a abordar

y ha sido complicado ordenar esta sociedad no es fácil entrar y tener que impulsar decididamente el objeto para la que fue creada que como se ha dicho es reducir el paro y crear empleo en sestao y en valle de trápaga sino empezar por poner orden corregir abusos

y no ha sido fácil señorías porque durante el mandato socialista se modificaron las mayorías y desde entonces fueron y son necesarias cuatro quintos para tomar las decisiones y adía de hoy el impulso urgente que decía el señor reyes que yo comparto absolutamente señor reyes ya lo hemos tratado y acordamos

y se va a comenzar en fechas próximas se está llevando a cabo el proceso de licitación del proyecto de relleno de urbanización con el proyecto de urbanización en la mano se verá el coste final de esas obras y por tanto el precio y el plazo de entrega de las parcelas

en esta empresa la última licitación se produjo en el dos mil nueve que fue el proyecto de urbanización que se dejó desierto desde entonces hasta ahora dos mil trece no se había licitado nada prácticamente

menos los gastos y es evidente que las cosas han cambiado de manera notable con la llegada a la sociedad de ibarzaharra de los representantes del partido popular estamos más cerca que nunca

y eso es lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho lo que no se ha hecho es hacer contratos laborales que puedan generar sospechas lo que no se ha hecho es vetar asuntos del orden del día porque

pero no tenemos derecho de veto y

instando a la sociedad pública ibarzaharra a cumplir las resoluciones firmes de los organismos competentes pero es que piensan ustedes pero es que cabe

se podían producir incumplimientos una obviedad señor reyes una obviedad desde nuestro punto de vista y nosotros señor maneiro queremos que se aclaren las cosas que han ocurrido

pero también es verdad que queremos que se cumpla lo que cada palo aguante su vela muchas gracias eskerrik asko iturmendi